o no sé igual es el pajarito el que funciona ez da bakarrik espainian edo nafarroan eaen ere

mantentzen cuando había elementos más que suficientes para tomar medidas mucho más contundentes que la defensa a ultranza de los miembros de los tribunales y el ataque a quienes denunciaban o denunciábamos cosa que siguen haciendo

honorabilidad de los tribunales reside señora murga reside en quienes denuncian esas prácticas

cuando menos amenazantes eta jarraitzen dut

en medicina intensiva en el que un jefe de servicio muestra su disconformidad y protesta por no ser miembro del tribunal y accedéis a introducirlo como miembro del tribunal

donde se filtra el examen del ivap y desviación por centros

reuniones extraoficiales urología se salta el anonimato con la tutela de osakidetza microbiología más de lo

digestivo desviación por centros y relación entre el examinador y los que aprueban cirugía plástica una opositora después de hacer el examen se retira de la ope y podemos seguir

todo esto se puede leer en los actas que hemos tenido a mano y qué hacen el departamento y osakidetza pues se han pasado olímpicamente las actas

a tenor de conocer que la juez yolanda varona había tenido que requerir

porque no había aportado toda la documentación a la fiscalía preguntamos a la señora consejera tiene intención de colaborar de una forma eficiente con la justicia en el llamado caso de las ope de osakidetza

hecho durante estos meses que una declaración de intenciones que es lo que en realidad le pedíamos incidió mucho en que ella no mantuvo aquella conversación con la doctora ubieta y sin embargo erkoreka ya había puesto fecha a cuándo se había producido hacía quince años es difícil creer además que no existiese esa conversación cuando el propio portavoz del gobierno salió hablando de que no había responsabilidad penal dado el tiempo trascurrido

pero tienen dificultades para admitirlo y yo lo entiendo pero lo que no entiendo ni se puede aceptar es que el gobierno esté dificultando

unos audios determinantes y que de manera intencionada no se mencionan ni en las transcripciones ni en los informes y eso no lo pueden negar porque es demostrable las transcripciones escritas de las declaraciones que se realizaron a diferente profesionales de osakidetza en la investigación interna de osakidetza tras las denuncias de filtraciones incluyen todos los datos que aportan los testigos es más los datos que se evitan dar y que son de interés son siempre los más comprometedores o las que hablan claramente de infiltraciones o directamente de tongo esos datos no aparecen en los informes de osakidetza

hablaba de ingente información y ya mostré que entraba en un pendrive y es que desde luego es comprensible que tras un año la tarea de encontrar escusas creíbles es cada vez más compleja

han llevado a cabo una colaboración insuficiente con la justicia yo diría intencionadamente exigua pero incluso sin entrar en valoraciones personales insuficiente tenía más importancia

como prueban los documentos internos que forman parte del sumario trescientos uno barra dos mil diecinueve que la de demostrar las filtraciones y esa es además la directriz que se toma durante toda la instrucción ver

es también el argumento que se utiliza para atacar a la oposición cuando desde luego no se tenía defensa ni argumento alguno para defender que no existían filtraciones y que era un invento para desprestigiar nuestro sistema público de salud desde luego para mí quien desprestigia

de forma mafiosa para colocar a los suyos para elkarrekin podemos también son grandes profesionales todos aquellos que sacaron un cero

trabajan de forma interina desde hace mucho tiempo en nuestros hospitales

han avalado comportamientos corruptos tapándolos para que no trascendieran eso

tras escuchar diferentes audios se observa como en varias ocasiones

de angiología incidieron en que el hecho de que el escrito de denuncia del doctor de egaña se hubises extendido había generado un impacto grande y un enorme daño

no las filtraciones de exámenes sino la filtración de la propia denuncia

cualquier actuación fuera de las normas establecidas la respuesta seria inmediata y firme en aquel entonces los ocho expedientes estaban en marcha

actuaciones irregulares y diría yo que en muchos casos cerca de la mafia qué se hizo se recogieron en el expediente no se trasladaron a la fiscalía no hubo algún tipo de respuesta inmediata y firme no desde luego

esa fue la estrategia inicial y con la que se continúa

dijo que se investigaría con rigor y transparencia dijo que si se demostraban anomalías o indicios de irregularidades se repetirían los exámenes solución en suspense

a la vista del sumario y de la arbitrariedad con la que se obró existen numerosos audios con las declaraciones de diferentes facultativos que hablan claramente de tongo o exámenes que parecen fotocopias en otras especialidades

que no había nada raro dijo que las medidas venían adoptadas por los tribunales tras conocer los informes que ahora sabemos que eran incompletos como traumatología

dijo que si se demostraban comportamientos susceptibles de medidas disciplinarias las tomarían y no las ha habido a excepción de las tomadas contra un miembro del tribunal por dar una entrevista a un medio de comunicación pero sin embargo la reunión del tribunal de traumatología en un hotel y que ahora

entre sus propios miembros quedó en apercibimiento

porque las declaraciones de la instrucción de osakidetza hubo vendetta

explica con detenimiento cómo habían sido favorecidos los colegas de los miembros del tribunal al que pertenece

por no haber sido beneficiadas esa información la tenía osakidetza y nunca hizo nada

así llama el departamento a todo lo que no quieren que trascienda lo interno

no lo han hecho en su totalidad o como se esperaba de un gobierno responsable y con interés en que se resuelva lo ocurrido pues todo esto es lo que nos siguen vendiendo con estos argumentos y esta estrategia que diseñó el señor darpón

y que el lehendakari no admitió y sin embargo tuvo que dimitir meses después así

a trabajar con rigor con rigor de verdad y colaborar activamente y con total transparencia en resolver las filtraciones de una vez del dos mil dieciséis dos mil diecisiete

bajo tinta correctora no es el mejor ejemplo de colaboración ni de transparencia

que comiencen a hacerlo de verdad y que la señora murga no mantenga la misma actitud de querer tapar y el mismo discurso que tuvo su antecesor y desde luego

nos preocupa que al margen de la necesidad que ha manifestado casi la totalidad de los instructores en cada uno de los interrogatorios de que todo se mantenga en el ámbito interno que no trascienda es que se haya acatado la forma que se ha hecho a las personas que denunciaron

pero que parece que para algunos miembros del gobierno y del pnv no son merecedores del prestigio que merecen

instructores asumiendo como propio el argumento de boicoteadores de las ope

facultativos como el doctor renedo hoy en día imputado refiriéndose a uno de ellos como bocazas o el doctor etxebarria jefe de servicio de traumatología de alto deba que aseguró que todo se habría evitado

no hubieran denunciado expresión por cierto celebrada con risas por los allí presentes

por cierto un poco de formación en perspectiva de género a los y las instructoras que hablan de marta macho como la chica y de roberto sánchez como el doctor sánchez

poniendo duda de su profesionalidad solo con el afán de querer desprestigiarla por sus declaraciones en una instrucción es por esto

se recoge la disculpa por parte de diferentes miembros del gobierno u

para que la práctica de las ope dopadas acabe algo que ni osakidetza se había atrevido a hacer no cabe seguir mirando a otro lado ya advertimos que el emperador caminaba desnudo
es hora de vestirlo mila esker eskerrik asko macazaga anderea

más de un año que conocimos las irregularidades en la ope de osakidetza dos mil dieciséis dos mil diecisiete

a la existencia de posibles filtraciones en los exámenes que se realizaron no tengo que recordar aquí me voy a repetir en alguno de los argumentos

sabemos han sido muchas en la alarma generada en que al final se ha frustrado con este escándalo la expectativa de muchos aspirantes noventa y seis mil personas que decidieron acceder a una plaza

se han depurado también responsabilidades responsabilidades políticas porque el caso a que se tuvieran que asumir por parte del gobierno responsabilidades en un escándalo como acabo de repetir de enorme envergadura y que afectaba y afecta

muy bien valorado por cierto por el conjunto de los ciudadanos vascos responsabilidades

del director de recursos humanos y del propio consejero de salud hay que decirlo otra vez que nunca ha habido precedentes en un escándalo

evidencia la envergadura del escándalo de la asunción de tantas responsabilidades en tantas personas del departamento

en personas concretas del departamento como el consejero y en osakidetza

los análisis psicométricos de la universidad de oviedo el informe del profesor rafael jiménez asensio la denuncia de la fiscalía

al juzgado de instrucción y desde el grupo popular vuelvo a reiterar hemos criticado

como la gestión que se ha hecho por parte del gobierno vasco de estas irregularidades hay que decir que en un primer momento negó el gobierno las irregularidades

incluso se echó balones fuera defendiendo la limpieza de todo el proceso selectivo

irregularidades y finalmente se ha actuado se ha asumido responsabilidades políticas

a rebufo de los acontecimientos y desde luego por la posición que ha mantenido aquí o hemos mantenido determinados grupos políticos por lo tanto volvemos a reiterar

y que el gobierno vasco se ha visto superado por los propios acontecimientos creo que nuestro grupo ha actuado con la absoluta

exigiendo el total esclarecimiento de los mismos y llegando

y la asunción de responsabilidades políticas que en su caso pudieran corresponder y hay que decir que han correspondido

de dicho ente público en lo que se refiere a la política de recursos humanos adoptando para ello las medidas que fuesen precisas ahora como todos sabemos hay una investigación

en calidad de investigadas otras de testigos y otras

en función de los testimonios también que se vayan produciendo

y que se depuren las responsabilidades penales que en su caso también pudieran corresponder se están investigando señorías

delictivas y tenemos que tener respeto y confianza en la actuación de la justicia este grupo desde luego así lo quiere mostrar una vez más en esta

no estamos hablando de meras irregularidades administrativas o que se queden en el plano administrativo pero como digo los tribunales dirán lo que tengan que decir

creemos que aquí está en juego la credibilidad de nuestro sistema muy dañado y es responsabilidad de este gobierno

duda que pueda recaer sobre el mismo realizando para ello todas las actuaciones precisas

y obviamente en la crítica en relación a la gestión de todo este asunto por parte del gobierno vasco nosotros consideramos oportuno presentar nuestro propio texto en el mismo hacemos referencia al cuestionamiento de la actuación ya no solo de los departamentos de salud

y osakidetza sino también del departamento de gobernanza pública y autogobierno cuya cabeza es el señor erkoreka aquí presente y en el propio ivap en el papel que ha tenido en la planificación de la ope

cuando señaló que quería una ope limpia y que por ello decía o se escondía ya en esas mismas palabras la intención de derivar al ivap la realización de parte de los exámenes por lo tanto tenemos que decir también

su responsabilidad pero en cualquier caso los tribunales también dirán lo que corresponde en este punto por ello queremos seguir instando a este gobierno a que adopte las medidas que sean necesarias para el total esclarecimiento de los hechos

en futuros procesos selectivos creemos también

organizativos también que sean necesarios según los resultados de procedimiento juridicial en curso también hemos instado al gobierno vasco

en la remisión de la información precisa para el desarrollo de la investigación judicial en marcha se adopte una actitud absoluta de colaboración con la justicia

la remisión de la información a la fiscalía se realiza la que se remite después de la aprobación de la moción

que se ha remitido toda la información relativa a los exámenes de la ope la fiscalía ha recibido de osakidetza toda la documentación relativa a la ope del dos mil dieciséis dos mil diecisiete estas son la afirmaciones que nos realizó

a propósito también de la contestación que nos dio en un pleno de control pero tenemos que decir que no es cierto que la fiscalía haya recibido toda la documentación relativa a la ope bi mila hamasei bi mila hamazazpi por eso hemos considerado oportuno instar a que se lo haga

para ello como ha sucedido en relación a la información que fue remitida en un principio llegados a este punto creemos oportuno defender nuestro texto desde luego creemos que se ajusta más

y sobre todo teniendo en cuenta que hay una investigación judicial en marcha no obstante pues en algunos puntos sí podemos coincidir con los grupos proponentes pero en otros

y a todas la última vez que hablamos en este pleno de este asunto yo hablaba de rosario de iniciativas y efectivamente uno de los grupos que hoy presenta esta moción ya nos anunció su intención de continuar con un plan marcado y la verdad que dicho y hecho

resulta complicado decir algo nuevo o algo que pueda aportar al debate

porque las posturas son las ya conocidas las explicaciones las hemos escuchado las hemos leído las hemos atendido estudiado discutido

y las discusiones las repetimos y parece que las repetiremos también hoy en muchas ocasiones parece que

y es la dificultad de atender a un asunto desde dos perspectivas tan contradictorias pero lo cierto es que la cronología de los hechos es una aunque se pretenda contar de otra forma parece ser que estas dos mociones que nos traen hoy aquí tienen como telón de fondo las transcripciones escritas de las declaraciones que se tomaron a miembros de los tribunales y opositores en el marco de la investigación interna aunque hoy se haya aprovechado esta tribuna para hablar de lo que ya se hablaba hace un año escuchadas a las dos portavoces tanto a la señora ubera como a la señora macazaga

pase lo que pase se explique lo que se explique con un consejero o con otra con una ponencia o sin ella es decir de poco o de nada sirve aquello a lo que nos comprometemos en este parlamento porque aunque que queramos decir lo contrario señora ubera sí se está cumpliendo la moción que aprobamos hace un año punto compartimos aquello que ya dijimos hace unos meses no vale hacer afirmaciones basadas en titulares y no sujetas a un criterio objetivo no se puede trabajar en torno

teniendo en cuenta la ponencia que por cierto decidimos crear entre todos desde el minuto inicial de este asunto

mientras que debería haber prevalecido el esclarecimiento de los hechos acontecidos poner en marcha un procedimiento tomando nota de lo que había sucedido y desde luego no politizar un proceso judicial que es lo único que ustedes llevan haciendo desde hace un año además tal y como dijimos en su momento

reconocer el trabajo de los y las profesionales del sistema público de salud y dedicar todos los recursos necesarios

y pudieran participar con las garantías necesarias debiera ser y es nuestro objetivo principal atendiendo a los puntos planteados por los grupos proponentes decir que cuando se habla de mala conducta por parte del departamento en este asunto es manipular los hechos por no definirlo de otra manera

a la fiscalía y no ser capaz de sostener esta afirmación además de afirmar un intento de obstaculizar la investigación de los juzgados

no pretendiendo hacer una rendición de cuentas sino una descripción de la realidad apoyándonos en hechos objetivos dieciocho

información remitida por la señora múgica a iniciativa propia sin ser requerida por la fiscalía veintiuno de septiembre la señora múgica vuelve a remitir información a la fiscalía sin ser requerida previamente incluyen informes finales y los análisis sociométricos de los cuatro expedientes a los que nos venimos refiriendo desde hace más de doce meses veintiseis de julio de dos mil dieciocho comunicación en relación con los hechos acontecido

tres de diciembre del dieciocho se aporta diversa información el preacuerdo de la mesa sectorial de sanidad suscrito con fecha veintitrés de junio

por el que se aprueban diversos criterios sobre inclusión de plazas adjudicación de destinos

certificado del acta de la reunión de la mesa sectorial del tres de julio del dieciocho

mociones presentadas por diferentes grupos parlamentarios relativas al esclarecimiento de las presuntas irregularidades e informe de pruebas selectivas de la ope hamasei hamazazpi veintiuno de diciembre

las actas de las reuniones que hubiera mantenido el tribunal calificador de anestesiología

ocho de enero del diecinueve contestación a requerimiento por parte del director general

al juzgado supongo que estos datos estas fechas y estos informes tampoco les servirán de nada

y en otras a petición de la fiscalía es una realidad lo quieran reconocer o no por tanto de qué estamos hablando se ha facilitado información a la fiscalía se ha obstaculizado hay opacidad o ustedes se empeñan en la primera frase que dijeron en la primera intervención hace doce meses porque lo que parece que ocurre aquí

ahora a una supuesta conversación o a unas transcripciones que también hemos podido escuchar los grupos que formamos parte del gobierno y por supuesto nunca se ha negado la entrega de nada ni antes ni durante ni después de que ustedes presenten iniciativas relativas a este asunto por otro lado ya hemos hablado

ya conocemos posiciones y de la misma forma que ustedes tienen su criterio respeten el criterio de quien en este caso no piensa como ustedes traen iniciativas al parlamento las pierden y punto no por traer y traer y traer vamos a acabar cambiando de opinión por tanto tal y como dije en uno de los debates de los múltiples que hemos tenido no simplifiquemos este asunto entre buenos y malos entre inocentes y culpables entre responsables y víctimas

y los protectores de lobbies o intereses partidistas que es donde acaban llevando todas las intervenciones por tanto y por concretar con sus mociones sobre la mesa

porque ha tomado decisiones de diferente índole ha colaborado con este parlamento y sus portavoces y con la justicia no vamos a pedirle al departamento que envíe la información a la fiscalía porque es exactamente lo que está haciendo desde el minuto uno

en lo que se refiere a la suspensión de procesos de resolución de la ope de médicos especialistas

no desaprobamos la insuficiente colaboración del departamento porque es faltar a la verdad y además lo saben otra cosa es que este asunto en este asunto prefieren jugar sin pensar en las consecuencias reales de determinadas

no vamos a instar al departamento a trabajar con rigor colaborar activamente porque es exactamente lo que están haciendo con lo cual y como decía al principio poco nuevo que añadir

la discusión parecen evidentes y por tanto por supuesto confiar en que la justicia actúe más pronto que tarde y si alguien ha cometido

tendrá que pagar con ello sea quien sea y desde luego creo que mi grupo parlamentario nunca se ha negado esto además quien tenga pruebas

no se puede decir esto se sabía esto se sabe y treinta años después parece que esto lleva oculto en los pasillos de los hospitales vascos pero dejemos de utilizar este asunto para mantener una vela encendida que ya no se sujeta no sabemos cuál será

pero sinceramente lejos de aportar no hacen más que enredar este tema nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

aipatzen duzue que se reprueba la actitud de insuficiente colaboración con la justicia que no ha puesto toda la información incluso se habla de que se ha intentado obstaculizar la justicia

no lo han argumentado suficientemente bien

de toda esa colaboración inicial de toda esa colaboración que se ha hecho una vez que estaba en tramitación la instrucción

para resolver las filtraciones una vez más es que a ustedes les da igual lo que ha sucedido realmente porque ustedes ya tienen sentencia

y parte ya sabemos que existen filtraciones lo que no sabemos es quién y cómo pues precisamente

para deducir que ha habido filtraciones guk hasieratik ez dugu ukatu filtraziorik

hitz egin duzue de trasladar todo el material incluidas las máquinas correctoras

que el gobierno vasco tiene que disculparse por las manifestaciones que se han vertido

hitz egiten duzue que se suspenda cautelarmente la resolución de los procesos excepto los de médico especialista pediatría hospitalaria ubera andrea hau tranpa egitea

gai hori hasta el esclarecimiento y extracción de conclusiones de qué ustedes ya han

existen filtraciones vale demuéstrenlo pruébenlo zuek esan duzue urtebete

si quiere podemos votar por puntos no tenemos ningún problema señora rojo le recomiendo y le invito a que lea

y lo analice con objetividad y luego lo hablamos begira guk behin eta berriro jarri ditugu frogak eta datuak

para terminar dos cuestiones una hoy os voy a pedir como pedir es libre

que no respondan con la tan recurrida respuesta de las encuestas de satisfacción y la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de

los únicos que cuestionan y que ponen en duda esa profesionalidad son ustedes son ustedes cuando defendéis un sistema de acceso corrupto

suspender y poner notas cercanas al cero a la gran parte de opositores que no son los elegidos ustedes defienden la profesionalidad

y humilla a otros y para terminar el fuego lo encendió el señor darpón con mentiras y la hoguera sin control porque claro una mentira lleva a la otra

ardieron los nombramientos de soto múgica y del señor

la verdad y la reparación mediante nuevas políticas

si quiere estableces esas nuevas políticas y si va a echar más leña más mentira

para que siga creciendo sin control eskerrik asko

de ope de fracking de lo que quiera pero no nos diga a la oposición si tenemos que traer iniciativas o no porque nos podemos sentar ahí

mire esta mañana escuchaba la radio y escuchaba a la señora consejera

es lo menos importante porque las filtraciones de osakidetza en realidad es un vox populi

estoy segura que está al corriente como el resto pero en su cargo es difícil de admitirlo

seguir trabajando en qué en tapar ocultar y mantener

algo que es innegable seguir negándolo eso es seguir trabajando porque es lo que hasta ahora hemos tenido

lo que salió de aquí se hubiera cumplido hoy no estaríamos así en elkarrekin podemos no queremos que el departamento siga colaborando

porque a fiscalía se ha mandado material pero sabemos que no y si no señora rojo puede escuchar a la juez instructora pero también el decreto de la fiscalía

los audios señor orbegozo están publicados por un diario digital eldiarioes hay los puede escuchar como los he escuchado yo pero ahí están están publicados me cuesta escuchar a la consejera en la radio diciendo

cuando está interesada en mantener una segunda prueba mal llamada práctica una prueba que en nuestras reuniones bilaterales se acuerda señora murga que aún no era consejera defendía a capa y espada una prueba que se ha demostrado que son la base de las filtraciones

no se vea negativamente afectada lo que hay que hacer es limpiarla de corruptelas y dejar de taparlas

no puede estar basado en campañas de relaciones públicas y marketing

todas aquellas personas que día a día trabajan en el servicio para toda la ciudadanía todas las personas

los facultativos fijos y los no fijos que son muchos personas que no les dan la oportunidad de pasar a una plaza estructural hasta que un dedo les señala

corrompe nuestro sistema público de salud y ustedes se están encargando de taparlo porque saben que existe y estamos por ayudar a que salga

tienen profesionales como el doctor arrazua que en su ímpetu porque nos creyesemos

puedes aprobar con un perfecto examen el práctico

teóricos perfectísimos que son absolutamente asesinos quirúrgicamente

maten esto lo ha dicho un señor que se dedica a ser jefe de servicio de osakidetza esta persona es la que tira por el suelo el prestigio de osakidetza no la gente que denuncia ope

yo creo que es momento ya de levantar la manta que todo lo ha tapado hasta ahora y nosotros hemos traído mociones tras mociones evidentemente para que esto acabe le hemos querido echar una mano primero al señor darpón y luego a usted aprovéchelo porque la enmienda que ustedes presentan

el parlamento vasco insta al gobierno a esclarecer con absoluta transparencia

la irregularidades detectadas en la ope de osakidetza para análisis

contenido de las pruebas realizadas y la elaboración de los exámenes derivan y en especial sobre los profesionales a los que este organismo haya contratado

no se enviaron deliberadamente a fiscalía porque lo que no se quería es que fiscalía diera ese decreto que hizo se quería evitar que se judicializase y que se quedara todo en lo interno y tapar y seguir manteniendo

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a dar traslado a fiscalía de cualquier indicio

se ha dado una información sesgada y de eso nos quejamos esa retahíla que usted ha nombrado sí se dio pero no se dio toda y lo que queríamos era colaboración absoluta

no tenga unas prácticas corruptas que usted usted usted y yo sabemos que existen y yo creo que ya es momento

gracias presidenta mire señora ubera y señora macazaga

analizado trabajado y escuchado porque he leído las actas

por lo tanto no me falten al respeto con el cumplimiento de mi trabajo que creo que quien me conoce aquí en esta cámara precisamente no me caracterizo por estar tocándome los pies vamos eso ya

que ponga en duda el desarrollo que hago de mi trabajo ni con las ope ni con nada porque

ese comentario dicho esto lo de presentar iniciativas señora macazaga claro que traen iniciativas es que

no ha entendido la diferencia entre un partido que forma parte de un gobierno que tiene una labor concreta y los partidos de la oposición esta parlamentaria que le habla que ha sido durante muchos años parlamentaria de la oposición

que yo también presentaba muchas iniciativas cuando formaba parte de la oposición

es traerlas intentar negociarlas para ganarlas

sirva para mejorar la vida de los ciudadanos vascos y cuando yo hablaba de rosario de iniciativas

sino que ustedes que hablan del prestigio de osakidetza son absolutamente responsables

sobre el sistema público de salud a eso me refería pero pueden seguir presentando y presentando que esta parlamentaria lo leerá lo analizará les escuchará e intentará negociar siempre que ustedes lo permitan

no somos los partidos que sustentamos al gobierno sino más bien ustedes mismas y les diré más yo creo que no se puede venir a una tribuna y hablar de régimen mensajes amenazantes actuar de forma mafiosa compartimientos corruptos desprestigio

porque todos hemos reconocido la importancia que ha tenido este tema y todos nos pusimos a trabajar y por eso pactamos siete de ocho puntos de una moción con ustedes

lo importante de leer las actas analizar los documentos y escuchar los audios es intentar abstraerse

y actuar con objetividad objetividad entonces no nos intentemos apoyar en determinas afirmaciones que se hacen en los audios

con nombres y apellidos y decir muchas de las cosas que se escuchan en esos audios y que lejos de estar sustentadas en pruebas que puedan ir a una fiscalía y ser

una prueba clave de delito son comentarios en los de bueno yo creía bueno pruebas no tengo bueno eso se decía

y eso ustedes saben que no lo dice ni uno ni dos ni tres pero no seré yo la que ponga aquí nombres y apellidos a quienes forman parte de una instrucción interna porque no me parece ni responsable ni justo y además me parece que esto no viene a cuento aquí estamos para mejorar el nuevo modelo de ope

dudo qué hacemos en esa ponencia si no se la creen si ustedes desprestigian esa herramienta que hemos creado en cada una de sus intervenciones si ya no saben a qué agarrarse si lo último es una conversación que alguien dijo que dijo y entonces si la consejera dice no lo dijo

mire ustedes han cogido este tema como una lanza en la que quieren sustentar todo lo que tiene que ver con el departamento de salud tenían un objetivo claro que primero fue la señora múgica

y mientras tanto están las personas que se presentaron a la oposición que paralizan sus vidas para presentarse a esas oposiciones que algunas acuden a esa

con notas hasta de la carrera porque se está poniendo en cuestión su profesionalidad y de esas nadie habla y es profundamente injusto y hablan de frustración hablaba la señora garrido frustración frustración de quienes desarrollan cada día su trabajo en los hospitales vascos

por cierto profesionales que atienden a cada uno de los ciudadanos de esta comunidad autónoma desde los pediatras a los niños hasta los que operan en quirófanos entonces creo que debiéramos

y cuando uno no tiene argumentos el argumento no es atacar a los partidos del gobierno pretendiendo decir que venimos aquí sin los deberes hechos el tema está más que trabajado me sé actas de memoria informes de memoria sé afirmaciones concretas con nombres y apellidos

y le diré señora macazaga y termino presidenta que efectivamente la oposición la labor es control al gobierno por supuesto y usted

y esta parlamentaria trajo una iniciativa traída por usted desde la sociedad para intentar solucionar un problema de salud a niños vascos

de lo que ahora dice que hacen los de la oposición y que cuando nosotros estábamos no lo hacíamos porque sabe que eso es mentira y desde luego lo que no voy a permitir es que se ponga en entredicho el trabajo que hace ni yo como portavoz de salud en este caso

porque como dije un día el que venga detrás que empate señora macazaga eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

deitzen da eta esaten du donde quiera que se encuentre el prejuicio

benetako gure ereduak emaitza hauek ditu nota siete coma seis sobre diez a la calidad de los servicios recibidos sesenta y dos por ciento

zuek zein portzentajetan zaudeten lo más valorado profesionalidad del personal sanitario

etcétera etcétera etcétera humanidad en el trato instalaciones y equipamientos hori gero ahaztu egiten zaizue

gracias presidenta lehendakari consejero consejeras señorías buenas tardes bueno después de esta sesión tan llena de cuestiones tan variopinta tan llena de temas distintos pues vamos a acabar con un tema de cultura

a través de nuestra moción poner algún deber al gobierno en relación con materializar sus líneas de cultura para

que podamos sacar si se decide votar a favor lo dirá y es que esta moción arranca de la interpelación que tuvimos con el señor

el pasado catorce cuando el consejero de cultura intervino

y para preguntarle sobre ver el seguimiento a los planes culturales del gobierno vasco y que podamos conocer y en ese sentido era

las intenciones del departamento en dar impulso a los instrumentos de cultura que tenemos sobre la mesa

también en este parlamento en la comisión el gobierno vasco

auzolanean habían pasado recordábamos en esa interpelación dos años desde que la comparecencia

estratégicas o las líneas de trabajo para la legislatura y donde dijo que él iba a dar continuidad al plan de kultura

aunque había que y refiriéndose al plan en concreto había que afrontar algunos cambios hablaba también en relación con algunas cuestiones que

sobre todo del departamento en relación con ese plan y por eso estamos aquí por eso planteamos esa interpelación sabemos que el gobierno ha ido trabajando y ha podido trabajar en ese desarrollo pero queríamos

cuestiones concretas y queríamos que se nos explicase de alguna manera el consejero hablaba de una segunda fase del plan

también hablaba de cuatro compromisos también hablaba de acciones o de programas o de intenciones culturales que están planificándose

que van a tener una continuidad en el tiempo y por eso visto que hay intención o visto que hay propuesta sobre la mesa queremos conocerlas y queremos

se llame como se llame pero cuál es y cómo se materializa a partir de los cuatro compromisos de los que él hablaba claro

en relación con los instrumentos que tenemos o que puede tener la sociedad para trabajar en materia cultural que era la cooperación interinstitucional dentro de lo que es el programa

esas patas y de esos compromisos culturales de planificación suponemos del consejo vasco de la cultura el elemento que está y que se reúne habitualmente

abordar esas cuestiones que también integra a órganos de la administración y también a otras personalidades y parte del sector cultural desde luego en una labor que tendría que ser pues importante e interesante la representación sectorial

cultural la representación sectorial y esa diversidad el otro día podíamos hablar de fragmentación que sí que también es verdad pero yo me quedaría más con la palabra

hay muchos colectivos y desde luego hay que

con esas cuestiones que tienen que ver con la coordinación con la estrategia y bueno y lo que era lo que formaba parte además de una de las cuestiones quizá del primer compromiso que el programa auzolanean que tuvo en su inicio allá por el dos mil trece

y sus análisis y sus propuestas de carácter cultural bueno pues a todo eso nosotros queremos darle una concreción y por eso habíamos pedido la interpelación y luego la moción y yo quiero recordar que el plan kultura auzolanean

tenía que ser un instrumento y fue un instrumento y se concibió como un instrumento después del plan de cultura que tuvo unos anteriores gobierno vasco o del contrato ciudadano por la cultura que también

y que quería que este programa kultura auzolanean

en relación con la cultura y tengo que recordar y lo hacía el otro día pero sí que yo creo que es bueno

que esos proyectos que se consideran cerrados pero que algunos vuelven a estar de actualidad hablábamos del impulso al observatorio

conocimiento hablábamos de fábricas de creación de políticas fiscales de vías de financiación

hablábamos de la etb y de difusión de contenidos culturales de varios sectores de la mejora de las vías de exhibición del arte vasco contemporáneo del

libro creación de la oficina de la música planes subvenciónales para el teatro hablábamos de muchas cuestiones la ley de documentos y archivos la ley de documentos y archivos que no se quedó

de kultura auzolanean sino que tiene que ser una fase porque tenemos pendiente además la ley de patrimonio

la biblioteca digital electrónica vasca de aquel momento mapas de exposición de

y continuaban algunas cuestiones muy importantes como el plan de fomento de la cultura

pensar la articulación sectorial la presencia de la cultura en los medios de comunicación

y los museos y los centros de arte las condiciones de trabajo de los y las creadores elemento muy importante que liga con las fábricas de creación y con el mapa y la cartografía de espacios de iteración de la comunidad autónoma vasca eso también como proyectos abiertos que estábamos pero

de este grupo parlamentario ese es el objetivo de la moción por dónde continuamos y por eso

en relación con las cuestiones que el otro día comentábamos y debatíamos el consejero y yo

a algunos y queremos verlos plasmados y hay muchos hay muchos hablamos de vez en cuando

de las letras la literatura la lectura las artes escénicas las artes plásticas las artes audiovisuales la cultura tradicional la música el patrimonio inmaterial

el patrimonio documental y los archivos del que todavía tenemos pendiente una ley en este parlamento

a pedir al gobierno y a instar al gobierno a través de nuestra moción para que presente

de tres meses porque queremos tener un instrumento y un documento para conocer por dónde van a ir esas líneas de actuación del gobierno para que se presente en el plazo de tres meses un documento de seguimiento y de desarrollo en la segunda fase del instrumento

y las líneas estratégicas en esa segunda fase cultural

lo consideramos también estratégico el otro día también habló el consejero de otros planes estratégicos de otras fases estratégicas y además con fechas determinadas en cualquier caso nosotros queremos dentro de esa que podría ser

o un punto y aparte o un punto y seguido mejor dicho de ese plan de kultura auzolanean y esa segunda fase conocer los proyectos y tenerlos definidos

analizarlos controlarlos valorarlos y también trabajar

con el sector yo en relación con la enmienda mesedez

legebiltzarkide bat hitz egiten ari da gracias presidenta de nuevo en relación con la enmienda de
adición que había el grupo eh bildu yo estoy de acuerdo con ella

el otro día en relación con esas líneas estratégicas y yo creo que hubiese sido pero

en la moción pero en la enmienda que usted ha presentado pero vuelvo a decir lo hare por una cuestión técnica porque si se vota

en cualquier caso prefiero abstenerme controlar que mi emoción sea aprobada porque en ese caso

antes de verano de un plan estratégico denominado cultura dos mil diecinueve dos mil veintidós

estratégicas de las actuaciones que como gobierno nos corresponde desarrollar e impulsar en los diferentes ámbitos de nuestra competencia hauek dira zupiria

izan dela inongo azalpenik eman gabe esan dudan bezala y lo último que conocen los y las miembros del consejo cultural vasco un vasco de la cultura trata del veintidós de junio de dos mil dieciocho en el cual en el marco de kultura auzolanean dos mil dieciocho dos mil diecinueve se les solicitaba que si tenían interés en participar en alguno de los proyectos pues que se enviasen unas fichas

se enviaba otra ficha además de esta primera que he citado de propuesta de nuevas líneas de trabajo o proyectos eta

y claro a nosotros y a nosotras nos parece bien la petición hecha por el señor barrio ya que es cierto que la acción del gobierno en materia cultural va un poco

que compartimos y es difícil percibir las líneas de trabajo que se desarrollan pero es que además si vamos a la web del departamento de cultura

o el plan de cultura de este gobierno nos parece bastante preocupante la falta de actualización de la misma el último informe de seguimiento que hay en la misma

lo único que se puede consultar es una relación un listado de proyectos abiertos y cerrados cuáles están abiertos y cuáles están cerrados y además desconocemos el grado

de dicho listado pero que la ley de documentos y archivos aparezca como cerrado repito la ley

pues ya nos lo dice todo hay muchos apartados

así que bienvenida sea la petición que recoge en su propuesta el señor barrio

al gobierno sirve para ordenar un poco estas cuestiones en el departamento pero para nosotros esto es una consecuencia no es más que

con una ausencia de líneas de actuación claras que estén bien secuenciadas y con sus respectivas evaluaciones

es una falta es una consecuencia de una falta de estrategia clara porque está muy bien muchas de las materias que se han llevado a cabo estos últimos años y así lo hemos valorado y

de cortapisas pues por ejemplo la organización de subvenciones la optimización de programas concretos como ha habido o el análisis de sectores culturales que se ha llevado a cabo a través del observatorio vasco de la cultura pero consideramos que en los últimos quince años ha cambiado mucho las cosas ha cambiado también mucho también el sector y que ya va siendo hora que el gobierno

la enmienda de adición que hemos presentado a la iniciativa originaria del señor barrio y ponerse las pilas no es presentar un documento con un título que recoja las palabras plan

o que recoja lo que este gobierno considera casi de manera unilateral lo que es estratégico

un proceso en el cual se pongan unas bases compartidas en lo que debe basarse el futuro plan estratégico de la cultura de este país y no hay que mirar demasiado lejos

han llevado a cabo procesos donde los cauces de participación han sido

muy notoria si vamos a ver la actuación en este sentido del gobierno de nafarroa el documento la resolución que da inicio

un nuevo plan estratégico cultural la fase uno y la fase dos

consiste en la definición de objetivos de líneas estratégicas y la metodología del plan estratégico de cultura de navarra en la fase tres se habla de

transversales y territoriales así como de las acciones necesarias en este marco de participación

observar un cuadro bastante exento con numerosas mesas organizadas con fechas datos concretos con temáticas concretas en villava casa de cultura se va a hablar sobre x sobre y sangüesa sobre tal

y se ha establecido y se ha diseñado todo un proceso con unos cauces de participación

de manera conjunta consensuada y participada por los diferentes sectores culturales pero es más una vez que se diseña se establece en este escrito en esta orden foral que da inicio al procedimiento que tras la celebración de estas mesas se elaborará el borrador del plan estratégico de cultura de navarra y se procederá a su publicación en el portal de gobierno abierto para la recogida de aportaciones ciudadanas

se culminará el proceso de elaboración con la aprobación del documento

por lo tanto como decía creo que no hay que mirar muy lejos para ver cómo se pueden hacer las cosas y en ese sentido nosotros hemos presentado

y por lo que me consta hasta el momento parece ser que partidos que sustentan el gobierno un gobierno que ha anunciado por boca de su consejero que en otoño tiene previsiones de presentar las líneas y las bases

pues parece ser que no van a votar favorablemente de manera favorable y es algo

no llegamos a comprender a qué puede responder lehen esan dudan bezala beharrezkoa da

sí gracias señora presidenta

buenas tardes a todos y a todas después de este intenso pleno algunos puntos más

también ha sido intenso poco me voy a alargar porque yo creo que los dos portavoces anteriores

exactamente cuál era el motivo y la causa que nos traía a esta moción el señor barrio lo dijo claramente

un tiempo de poder obtener una información sobre cómo

los resultados de kultura auzolanean y el propio consejero contestó favorablemente el señor

y ahora tenemos una moción cumplimentada puesto que el gobierno se ha comprometido ya en la interpelación a través del propio consejero a facilitar

sobre lo actuado hasta ahora y también a remitir a este parlamento y a presentar ante el mismo lo que son las líneas que pueden definir la estrategia para las próximas actuaciones de este programa todos sabemos lo que es kultura auzolanean todos sabemos los

sobre los que actúa la nueva gobernanza la interlocución entre las distintas instituciones y con la colaboración público privada y la actuación

de lo que tiene que ser la gestión cultural que es mucha la que facilitan nuestros agentes culturales en nuestro país yo creo que es que es muy difícil si hablamos de la interpelación

era una interpelación informativa que se le contestó que le iban a remitir esa información y además se va a remitir también las líneas estratégicas de cara al futuro es verdad que luego hay una

o la lectura de la interpelación que ha explicado

el señor estarrona lo que dijo el consejero yo entendí que el consejero se comprometía a lo que le pedía el señor barrio

de lo actuado en ese programa hasta ahora y a trabajar con esos principios de gobernanza gestión compartida colaboración público privada de cara

territorios cercanos que ha citado el señor estarrona

a la moción puesto que no puede ser de otra manera sabía usted que iban a cumplir lo solicitado en la interpelación a lo mejor incluso no teníamos que estar hablando de la moción porque sabía que se iba a complementar pero una vez presentada

hay que hacer esa valoración y además de hacer esa valoración sería conveniente y así lo ha asumido el departamento que se

esas líneas estratégicas porque cuando un parlamentario lleva razón no tiene por qué el gobierno no dársela y es lo que vamos a hacer votando a favor de la misma muchas gracias

nos toca terminar hoy el pleno ordinario el último pleno del periodo de sesiones con una iniciativa del señor barrio relativa al desarrollo del programa cultural auzolanean como herramienta principal de la política cultural del departamento

para empezar hay que dejar claro que el departamento de cultura se ha caracterizado esta legislatura por su apatía y por su inacción en todo lo que tiene que ver

se mueve por inercia y sin iniciativa y la moción de hoy es un ejemplo perfecto el grupo popular presenta una iniciativa para hacer seguimiento del programa

como va a ser dentro de unos minutos se acaba aprobando con los partidos que sostienen al gobierno

por el que se seguirá haciendo lo mismo que se hacía presentar programas y líneas pero

es que ahora la van a firmar varias parlamentarias y en eso tengo que reconocer el talento que usted tiene señor barrio para parecer que hace oposición

del gobierno vasco con la cultura porque parece que la cultura que es lo que sí nos importa a nosotras aquí no le importa a nadie nosotras ya

a este parlamento trajimos una propuesta junto con colectivos del ámbito de la cultura para acordar y llevar adelante un pacto vasco de la cultura

para evaluar la política cultural de los últimos años empezando evidentemente por los planes programas y líneas estratégicas y en esto tengo que reconocer también otro talento el del señor zupiria que es experto en enumerar de forma pormenorizada

ya que las políticas que aplica el departamento del que es responsable y que él lidera son ineficaces a todas luces y es sorprendente porque hay

diputaciones y ayuntamientos donde se han llevado a cabo planes estratégicos y además con procesos participativos y en cambio a nivel autonómico ni saben ni contestan

se dedican a enumerar y la enmienda que nos ha traído hoy el señor estarrona es una reivindicación que ya se había puesto sobre la mesa dentro de la comisión de cultura una comisión que da la impresión muchas veces que se mantiene al margen de la realidad

en euskadi y entendemos que hay un problema general en este departamento donde sobre el papel todos son planes y proyectos maravillosos cuando uno escucha las respuestas que muchas veces cuando se le interpela o se le pregunta

la verdad que se queda muchas veces satisfecho pero es que en la realidad no se cumplen

nosotras lo hemos dicho y lo hemos planteado muchas veces creemos en otro modelo cultural y además la situación de la cultura en euskadi pasa

donde realmente la cultura se ponga en el centro nosotras siempre hemos entendido

además de recortes y perdida de agentes culturales como consecuencia al principio de la crisis económica y especialmente en los ámbitos que se han citado aquí

en vivo de la literatura o del euskera y como

y las propuestas de política cultural sobre el estado de la cultura

la política cultural vasca tiene escasa centralidad en las políticas públicas lo que dificulta la constitución del sector cultural vasco en el mercado globalizado en el que debe competir en inferioridad de condiciones

es necesario un acuerdo basado en el consenso que garantice la presencia de la cultura

que garantice unas condiciones laborales y profesionales dignas y en esta cuestión ya hemos hecho hincapié muchas veces porque hemos traído a esta cámara la situación de precariedad en la que viven

de espacios culturales que dependen de la administración pública y por supuesto que tenga como objetivo la apuesta por el fomento cultural tanto en su vertiente económica

entendiendo siempre que la cultura es un derecho y un bien común y ante esta

entendemos que nosotras creemos que esta moción lo único que hace es seguir dándole

que es verdad que no actualiza porque lo que ha comentado el señor estarrona cualquiera de ustedes lo puede comprobar

nosotras cuando una lee la moción claro que estamos de acuerdo

señor barrio es imposible no estar de acuerdo con sus mociones claro sobre el papel porque luego lo que hacemos es se quedan en un cajón y no pasa absolutamente nada y creo que la cultura de euskadi no se merece eso y creo que además lo que está pasando es que estamos reiterando temas porque estamos ante un ámbito como es el de la cultura hay muchos agentes y muchos colectivos del sector

un pacto una participación y un cambio de modelo y se está haciendo oídos sordos y creo que este tipo de mociones

el seguimiento y todo lo que sea exigir el desarrollo de unas políticas culturales que como ya he dicho suenan muy bien cuando se leen no podemos estar en contra si bien la enmienda que ha presentado el señor estarrona evidentemente nos parece más adecuada porque es una cuestión que nosotras ya habíamos abordado

establecer un proceso para un pacto de la cultura porque parece que este departamento ni tiene

ni sabe para dónde va ni parece que le importe así que

no nos va a quedar otra que aprobar

que apoyar ambas iniciativas pero sí que queremos dejar

en nuestra intervención que el departamento de cultura necesita un cambio de rumbo y eso no solo pasa por enumerar planes proyectos

crear un proceso participado con los agentes del sector para que realmente el plan tenga algún sentido y la cultura sea un derecho

en base a la voluntad manifestada por el propio consejero señor zupiria

origen a esta moción cuando literalmente vino a decirle yo creo que no tendríamos

de diferentes documentos que se han elaborado hasta el momento y de otros que se puedan producir en los próximos meses

lan txukun bat egiteko yo diría que es una estrategia clara sólida a pesar de no tener un plan

entendido como tal es una estrategia clara y sólida

barrio jauna zerbait esan nahi duzu sí muchas gracias presidenta desde el escaño sobre todo para
agradecer a los grupos parlamentarios que vayan a suscribir la moción su apoyo y decirle a la señora garcía

o sea el trabajo lo hago yo detecto un déficit pido explicaciones exijo un trabajo al gobierno parece que se va a apoyar y eso parece que no es nada al final he cumplido con dos misiones mi función de control al gobierno a través de una interpelación y la función que tiene la oposición de impulso a través de una moción que se va a concretar

además que le he dado a ella la opción de ser crítica también con

de la moción o sea que yo creo que he cumplido hasta tres funciones en una misma actuación parlamentaria en cualquier caso

lo que vamos a aprobar que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que presente en el plazo de tres meses un documento de seguimiento y desarrollo

llamado segunda época del instrumento kultura auzolanean que todavía no lo tenemos en el que se describan los proyectos que en el programa tiene previste abordar y las

hecha esta moción yo creo que además concreta muy bien lo que hemos pedido al gobierno

eskerrak ematea carmelo barrio jaunari por haber solicitado a este gobierno que haga un excel muchas gracias señor barrio eta

eskerrik asko estarrona jauna euskal sozialistak romero andrea bertatik gracias presidenta si me permite desde el escaño

se consiga hacer un compromiso del gobierno

las líneas estratégicas en todo caso no quiero acabar que sin decir que

porque no he visto ninguna crítica de todos y todas las portavoces

de gestión que se realiza en kultura auzolanean yo creo que todos partimos de que esa colaboración es necesaria de que esa gestión participada

y pues necesitaremos ajustar los tiempos tanto ahí como en la comisión porque yo creo que la comisión también hemos compartido estos principios